egun on lehendakari jauna sailburu jauna legebiltzarkideok egun on denoi bien señorías hoy estamos hablando de un tema

y la forma de cobertura este es un tema que si tiene importancia en épocas de bonanza no digamos en los momentos en los que vivimos actualmente

el tema del trabajo y su cobertura es crucial no hablamos del trabajo evidentemente estable que todo el mundo sabe cómo se puede acceder a él que es mediante una ope

estamos hablando de esa otra parte de la oferta de trabajo

que no está ocupado por personal fijo y estable probablemente

pero no es desdeñable para quien aspira a un trabajo digno y de calidad

a estos puestos de trabajo y de qué puestos hablamos pues hablamos de puestos vacantes algunos temporalmente

son de nueva creación y hasta que se oferte una ope se deben ofrecer en una cobertura temporal o hablamos de vacantes por

fija evidentemente se deben de cubrir temporalmente también hablamos de vacantes

y que por lo tanto tampoco se pueden ocupar más que temporalmente

bien por sustitución de vacaciones enfermedades cursos permisos maternidad etcétera es decir todos ellos trabajos de cobertura temporal

de acuerdo a los datos que nos han llegado esto qué significa y qué requiere

y por otro lado una lista única y clara de aspirantes ordenados por puntuación de meritos esto que parece tan claro tiene evidentemente problemas en osakidetza y los problemas son fundamentalmente

es decir tendría que existir una lista única por categorías profesionales y especialidades accesibles para que cada persona aspirante a un puesto de trabajo se pudiera ver reflejado en esa lista conociera su situación y pudiera consultar esta posición en cada momento en la lista

esto requiere la publicación de las listas en la página web de osakidetza

de llamamiento diario con actualización automática a partir del volcado de datos lo que permitiría que cada consulta que cada persona pudiera consultar incluso

esto no es nuevo no es difícil lo hacen ya otras comunidades autónomas por ejemplo el servicio andaluz de salud que tiene en su página web aparecen estas listas

el orden de llamamiento de cada uno de los centros y por cierto hay más de setenta organizaciones de servicios y más de dos millónes de solicitudespresentadas es decir manejan un volumen de datos bastante más importante que el de euskadi y que evidentemente solo se puede hacer de forma hacer de forma digitalizada aprovechando las nuevas tecnologías lo mismo que

tecnologías para la cita previa o para otra serie de campos en los que se ve cada vez más claro que las nuevas iniciativas tienen un sitio

este campo también nos parece necesario utilizar como digo las nuevas tecnologías

osakidetza resolvería el principal problema de las listas de euskadi su falta de transparencia otro problema que tiene el sistema en euskadi es la falta de actualización o la actualización vamos a decir restringida

cuya celebración no depende de los aspirantes a un empleo

estas opes que en algunos casos la periodicidad es de cuatro a cinco años

pero en definitiva como décimos no está al alcance de los aspirantes sí se actualizan algunas listas anualmente como son las listas de facultativos de enfermeras y de técnicos sanitarios porque hay una sentencia

precisamente a esta actualización lo que significa entonces que hay un problema de injusticia y de discriminación porque hay un grupo de profesionales que sí tienen acceso a una actualización anual

no gozan de la misma posibilidad por lo tanto como décimos el sistema de actualización es injusto porque no depende de los aspirantes el incorporarse a una lista

y es discriminatorio porque unas categorías lo pueden hacer y otras no

aspirantes a estas listas porque hasta que no se presenta una ope no tienen acceso a ellas aquí de nuevo podemos comprobar que hay otras comunidades autónomas que sí actualizan anualmente sus listas y de nuevo acudimos a andalucía y al servicio andaluz de salud

de todas las categorías y publica las nuevas listas actualizadas

el personal que ya estaba incluido en ellas puede actualizar sus datos anualmente a través del sistema informático y quien quiera incluirse también de nuevo lo hace a través del sistema informático

no es correcto y es injusto también en nuestra enmienda acordada con el grupo eh bildu proponemos que se incorpore

es decir que dentro de las ofertas de trabajo hemos dicho que debe de existir la necesaria información sobre los nuevos puestos de trabajo

la creación de un plan de empleo en un plazo máximo de tres meses que contenga los objetivos específicos de creación y dotación de nuevas plazas por ejemplo

las consultas externas del ua también creemos que va a proceder

la dotación de nuevas plazas y si es así que se comprometa a su publicación en el plazo de tres meses para que señorías los aspirantes a estas plazas conozcan la oferta real de plazas que tiene osakidetza y puedan efectivamente

finalmente comentarles que hemos retirado el punto cuarto de nuestra enmienda original

antes de que el parlamento ya se pronunciara sobre la derogación del decreto ciento setenta y tres barra dos mil trece una vez votado y aprobado evidentemente solo esperamos que el gobierno acate el acuerdo mayoritario de la cámara

y que incluso acompañara a este acatamiento medidas anticrisis de fomento del empleo público

entre el grupo pnv y pp nos parece que no envía al colectivo de aspirantes

enviar los grupos que hemos acordado en nuestra enmienda que es un impulso claro a la transparencia a la actualización a la información y al plan de empleo

señor lehendakari miembros del gobierno bien en relación con la proposición no de ley que presenta el grupo eh bildu tenemos que decirle a la señora ubera que de verdad a usted

a usted y a su grupo las listas de contratación temporal de osakidetza

ustedes les da igual a ustedes les gusta

mediático meter mucho ruido las pancartas

pero nada más ninguna seriedad las preocupaciones por este país las suyas

las del empleo el desempleo no sus iniciativas van por otro lado bien

en cualquier caso hay que tomar posición sobre esta iniciativa puesto que

algún texto por esta cámara y lo que se ha presentado hoy creo que el punto de la racionalidad del sentido común de la proporción

mi grupo ha firmado con el grupo nacionalista que es una enmienda exigente pone trabajo al gobierno vasco para que acuerde la mejora de la gestión

de un grupo de trabajo con las organizaciones sindicales y con el fin de identificar y consensuar las medidas necesarias para garantizar la transparencia la accesibilidad de las mismas y su correcto funcionamiento nosotros queremos que eso se haga

de todas maneras por parte de cualquier gobierno democrático y más en estos tiempos profundizar en esta que afecta al empleo público y a preservar las condiciones de igualdad las condiciones de objetividad en el acceso al mismo y por ello entendemos que lo menos importante

y lo más importante es que se haga efectivo ese trabajo cuanto antes que si son seis meses pero el acuerdo es amplio

ya sería lo mejor en este caso está claro que en esa línea de la enmienda de transacción que defendemos baja a las claves del acuerdo en la mesa sectorial de sanidad que identifique los criterios de acceso a los nombramientos y el proceso de elaboración y gestión de las listas de contratación temporal y también

articule las medidas para mejorar la accesibilidad la publicidad la información que se ponga a disposición de las personas interesadas por otro lado establece

deba de adoptar las medidas a corto plazo para mejorar la publicidad la transparencia y la accesibilidad de los medios de comunicación y de los sistemas de información

interesadas en esas cuestiones en ese empleo en esa contratación creo pues que con ello garantizaremos lo que pide la proposición no de ley proponente que lo hacemos con un mejor acomodo a tiempos a cuestiones a concretar que exigimos al gobierno actuar en favor de un mejor funcionamiento y gestión de las listas de

como en el acuerdo y la mejora de los procedimientos y de la transparencia nosotros también sabemos nosotros también conocemos que el gobierno

a abordar este tema con el mayor rigor con la mayor seriedad entrando de verdad en el asunto y proponiendo medidas

ese acuerdo esos consensos necesarios para que esto sea así además al gobierno le conviene hacerlo así le conviene hacer ese análisis yo creo que es una asignatura pendiente

le conviene hacerlo así y que en ese sentido confiamos en que lo haga nosotros desde el grupo parlamentario que represento desde luego que en este tema estaremos atentos

esta exigencia que queremos hacerle al gobierno se cumpla y vaya por el camino correcto entendemos que también hay dos cosas la exigencia la obligación

iniciativa que nosotros queremos que el gobierno cumpla y las propias necesidades del gobierno que además le conviene que sea así en momentos sobre todo como este y hablando además

la contratación temporal en osakidetza como ha dicho la señora ofrece una importante casuística es muy diversa como ya lo ha manifestado y lo ha detallado y por ello

el gobierno y la mesa de trabajo que se genere para esta cuestión tiene que ser un trabajo exhaustivo tiene que ser un trabajo riguroso y por eso exigimos que se haga sobre unas bases

en esa mesa sectorial de la sanidad con las organizaciones sindicales y con el conjunto de departamento y de osakidetza yo creo que esa sea la clave fundamental esa sinceridad esa vocación de un acuerdo para esta cuestión

o por lo menos debe de mejorarse sustancialmente está claro que en el punto cuarto de la transacción que firma el partido socialista

es interesante pero corresponde a otro debate al que nosotros entraremos con gusto porque habría que concretar mucho mejor cuáles serían los elementos claves los que instar al gobierno a la hora de elaborar un plan

y que no una declaración puntual con otro fin que es el que pretende la iniciativa

podría ser tratado en este parlamento con entidad propia porque es una cuestión que se separa un poco

son claves distintas que desde luego que nosotros podemos debatir

trabajo y dar al gobierno también mandato por parte de este parlamento desde luego no nos oponemos a ello así que tanto ustedes como el resto de los grupos si ese tema hay que volver a traerlo

quieran en definitiva nosotros presentamos la enmienda de transacción

el análisis de las necesidades el consenso en la mesa sectorial en el acuerdo en favor de la contratación temporal en claves de transparencia de objetividad de igualdad
y en ese sentido pedimos el voto a esa enmienda de transacción muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

nuestro grupo por tanto comparte la necesidad de mejorar todo aquello que sea mejorable y que no se pudo hacer

de que se tomen las medidas oportunas para lograr una mayor transparencia

que la oferta pública de empleo convocada en el año dos mil once va avanzando y a la vista de la necesidad de elaboración de nuevas listas de contratación temporal con nuestra enmienda

la transparencia en la accesibilidad en la gestión de la contratación temporal por un lado

incluya también la gestión de las listas de contratación y para ello impulse la construcción de un grupo de trabajo con la participación de los representantes de los sindicatos

creemos conveniente que dicho grupo de trabajo analice el funcionamiento actual de las listas para poder adoptar las medidas adecuadas

el proceso de elaboración y gestión de las listas de contratación temporal así como la revisión

asimismo en caso de que sea necesario que se adopten medidas al objeto de facilitar el acceso a la información de las personas interesadas o de los representantes de los trabajadores o medidas que permitan a las personas inscritas en las bolsas

el estado de la contratación temporal de su situación es decir

y el correcto funcionamiento de las bolsas hori izan da beraz

presidenta buenos días a todos tengo que

tratar de impedir que se detengan a delincuentes no puede ser considerado un acto pacífico

y respecto al tema que nos ocupa en este primer punto aunque seguramente sea menos importante que lo dicho antes

general entre todos los grupos en torno a este asunto en fin finalmente por razones que tampoco llegamos a entender demasiado bien no ha sido posible

de transacción y debo decir que leídas las dos enmiendas transaccionales presentadas y habiéndolas escuchado habiendo escuchado

sensata y centrada la enmienda firmada por el grupo popular y por el grupo nacionalistas vascos por lo que será la que finalmente apoyaremos

parece extraño incluso metido con calzador el punto cuarto de la enmienda transaccionada firmada

eh bildu y el grupo socialistas vascos cuando se plantea un plan de empleo creo que este es otro debate

en esta enmienda transaccional que han firmado en todo caso ya digo nosotros firmaremos la enmienda transaccional

y el grupo nacionalistas vascos esperamos que sirva para mejorar la gestión de las listas de contratación temporal

un problema que los gobiernos anteriores no resolvieron tampoco lo resolvió el gobierno socialista anterior

y esperamos que el nuevo gobierno pueda resolverlo

nuevas iniciativas en el futuro para que pueda ser resuelto cuanto antes y dicho esto

me despido de antonio basagoiti para decirte antonio que tengas suerte que te vaya muy bien que seas feliz que te vaya muy bien a ti y a tu familiar y que tengas suerte en todos los proyectos personales que a partir de ahora abras

que lo hagas con toda la dedicación del mundo que lo hagas con toda la pasión y que efectivamente sobre todo seas feliz tú y tu familia

no se si bien pero estoy seguro que hablarás mucho de upyd e incluso de rosa díez

tendrás en el pensamiento a un partido político humilde y sencillo como el nuestro que en los últimos tiempos creo que te ha hecho pasar algunos malos momento no ha sido nuestra intención nunca hacerte pasar malos momentos hemos compartido como bien sabes algunas cosas algunas defensas y en todo caso antonio

señor barrio el ladrón cree que todos son de su condición

su grupo y que ha utilizado hoy usted mismo siempre son excusas para no entrar en el fondo

bien me quiero quedar con las coincidencias tanto en los discursos como en las preocupaciones presentadas por todos los grupos

de transparencia en las listas y la necesidad de la actualización de las listas además de ello en la creación de un grupo de trabajo en la que intervengan los representantes de personal

también creo que hay consenso en el tema de la complejidad de las listas pero solo por la cantidad

y que por lo tanto hay que utilizar las nuevas tecnologías evidentemente para poder resolver el problema

efectivamente hay tres grupos que consideran que el plan de empleo no debería haberse presentado en esta iniciativa como si un plan de empleo no fuera realmente una oferta de trabajo que tiene de entrada cobertura temporal de entrada cobertura temporal porque ya décimos que una ope

una acumulación de vacantes que requiere consenso que requiere una elaboración mucho más compleja y larga no se hace cada año y sin embargo

por lo tanto creo que es absolutamente oportuno hablar de ello en este momento y hay una cosa que me llama la atención en la enmienda de transacción firmada por el grupo nacionalistas vascos y partido popular en la que habla de acordar en la mesa sectorial

no estamos de acuerdo desde toda la vida requisitos y méritos y por lo tanto colocación en la lista en el orden de puntuación

no creo que haya que volver a revisar los criterios de acceso

nos digan que existe otro requisito u otro mérito

no creo que haya volver a estudiar los criterios de acceso al puesto de trabajo o al nombramiento aquí se habla de nombramientos y de puestos de trabajo no entiendo
hay que revisar los criterios de acceso creo que han sido siempre objetivos y que deberían seguir siendo objetivos nada más y muchas gracias eskerrik asko

tiene cien años de perdón y el grupo popular lo que querrá siempre es desenmascarar sus estrategias

porque están disfrazadas porque a usted no le interesan las listas temporales

a usted no le interesan los trabajadores a ustedes les interesan sus fantasmas

sus dependencias que ya sabemos todos cuáles son el tema de hoy nos importa lo suficiente e importa lo suficiente a esta cámara como para no dejarlo en sus estrictos planteamientos y por eso nosotros hemos hecho uno alternativo

ganador nosotros hemos planteado una importante instancia un mandato al gobierno sabemos que el gobierno se va a comprometer nos lo ha dicho

de ese compromiso que hemos firmado nosotros entendemos que es la fórmula clave la que hemos firmado nosotros para dar transparencia para alguna gestión

en el acuerdo lo fundamentamos en el consenso en el consenso entre los gestores de la sanidad pública vasca y de las organizaciones sindicales de los representantes de los trabajadores esa es la clave para mejorar todo lo que estamos pidiendo que mejore y desde luego ahí está yo creo que

habla con claridad de impulsar la creación de un grupo de trabajo junto con las organizaciones sindicales en el ámbito de la mesa sectorial de sanidad identificar y consensuar las medidas necesarias para la mejora de la gestión de las listas de contratación temporal de osakidetza es decir damos una instancia al gobierno décimos cómo en una mesa de trabajo buscando el acuerdo yo creo que esa es la clave fundamental y no decirle exactamente todo lo que tenga que hacer ahí identificarán harán el análisis de situación identificarán los problemas

que todos conoceremos y que entendemos podremos aprobar o criticar después acordar en la mesa

las medidas para mejorar la accesibilidad publicidad acordarlas en esa lista

sectorial de sanidad y desde luego en corto plazo por eso

cómo mejorar todas esas cuestiones y como hacerlas más cercanas a las personas interesadas

yo creo que hemos acertado con la firma de esta enmienda de transacción yo creo que es un buen camino no se separa tampoco tanto de la iniciativa no sincera inicial

seguiremos trabajando en esta línea analizaremos la actuación del gobierno y desde luego en lo que comentábamos antes del punto cuarto de la enmienda de transacción de psoe grupo socialista y bildu pues entendemos que es interesante pero correspondería quizá mucho mejor ubicarlo en otro debate con características más específicas porque se puede hablar mucho más
que de un punto aislado dentro de una proposición no de ley que habla de otras cosas muchas gracias eskerrik asko barrio jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den orbegozo jaunak dauka hitza

precisamente lo que introdujo el anterior gobierno socialista en su acuerdo como criterio de acceso

la oferta pública de empleo y eso es lo que pedía eh bildu que se revisara o que se tomara alguna decisión al respecto entonces es un tema que ha generado muchas quejas y lo que nosotros

a este parlamento a esta cámara establecer o concretarlos por eso nos referíamos a ello por lo tanto bueno como hemos reiterado anteriormente

temas muy concretos que corresponde a la mesa sectorial trabajar muchas gracias eskerrik asko orbegozo jauna

egun on guztioi la iniciativa que presenta hoy el grupo socialista pretende que avancen los tramites para poner en funcionamiento

paralizado desde que el partido popular dirige el gobierno de españa

de esta iniciativa que creemos que tienen mucha importancia porque si estamos

por el desarrollo regeneración urbanística y fomento del empleo en la margen izquierda sestao

es un caso especial actualmente tiene el veintisiete coma uno por ciento de desempleo la tasa más alta de euskadi sufrió una reconversión industrial que le ha producido unos efectos

como son un paro estructural y la degradación de muchos barrios históricos

tiene una pérdida de población desde mil novecientos setenta y cinco que tenía cuarenta y cinco mil habitantes hasta ahora con unos veintiocho mil ochocientos treinta y uno

de jóvenes del municipio hacia otros municipios y

municipales por eso todos los esfuerzos durante muchos años

se han dirigido a la puesta en valor especialmente de terrenos industriales ociosos como es en el caso que nos ocupa de provenientes del cierre de altos hornos y de babcock se hace así

en dos mil siete por impulso de distintas administraciones todas las que pueden concurrir

y ayuntamiento de sestao impulso que tiene durante gran parte del período del dos mil siete al actual

una mayoría absoluta en el consejo de administración del partido socialista es decir el

en el ayuntamiento de sestao en el gobierno vasco en el gobierno de españa del partido socialista ha supuesto realmente un impulso importantísimo continuado a este polígono empresarial que ha contado también y es de agradecer con el impulso de la diputación foral de bizkaia y el ayuntamiento cuando ha quedado en otras manos esperamos que

con ese mismo impulso que creo están haciendo este parque empresarial es un intento como decía

de creación de empleo y de contribución a la regeneración urbanística de sestao se trata de urbanizar esos terrenos demoler lo que había reurbanizarlos

industriales del sector terciario que permitan rejuvenecimiento de población y creación de empleo la previsión son la creación de ochocientos cincuenta empleos directos y mil indirectos en total

empleos actualmente la situación del proyecto es que tiene

tiene un informe de viabilidad acreditado incorporado al expediente y tiene una deuda por los terrenos adquiridos a sepides nueve coma ocho millónes de euros perfectamente asumibles tiene todos los planes prácticamente todos los planes aprobados cuando

a los anteriores tenía únicamente pendiente de aprobación el proyecto de

con los pliegos preparados y la licitación parada a partir de ese momento y tenía también

los pliegos preparados la licitación también pero está parada es decir no se ha producido en más de un año

desde esa llegada ningún avance y por eso estamos hoy aquí

un empeño de todas las administraciones que venía siendo que responde a una necesidad por las circunstancias de sestao y mucho más en un momento

que estamos sufriendo se paraliza un proyecto viable que está en marcha y que solo le falta la licitación de dos proyectos y la aprobación del pau del plan de adecuación urbanística que eso es

entonces no acabamos de entender por qué

esa licitación sigue parada cuando hay demanda además de empresas que quieren instalarse alguna aburrida se ha ido pero hay otras que

a la puerta del parque para incorporarse una de ellas es

que es una empresa importante de bricolaje que ha solicitado

y está estudiando la documentación hay un acuerdo con

las empresas públicas de zorrozaurre para traslado de algunas de esas empresas el posible traslado a este parque está el interés

expreso en este parque y todos esos proyectos están parados

no se puede licitar los dos proyectos que quedan por aprobar para que eso siga adelante hay que tener en cuenta que la aprobación de las actuaciones en el consejo de administración necesitan

y por eso aunque los representantes del gobierno central no tienen mayoría sí tienen la posibilidad de vetar simplemente negándose

de los votos para aprobar las actuaciones que estoy comentando si ahora mismo el consejo de administración que se celebre próximamente diera luz verde y para eso estamos aquí para instar al gobierno de españa

para que siga parado así un proyecto de estas características si ahora mismo

y se avanzara a finales de dos mil catorce estaría la urbanización terminada y

compromisos de empresas para su instalación con el consiguiente adelanto de fondos para facilitar ese proceso de urbanización progresivamente

repito que no acabábamos de entender ni siquiera conceptualmente

imprescindible para sestao en un momento de paro que ayuda a la regeneración urbanística de sestao que rejuvenece la población que crea empleo

contribuir a ampliaciones urbanas regeneraciones urbanas

notorios es difícil de entender salvo que la deriva del partido popular haya llegado en el gobierno de la nación a decir allá donde haya

yo no gasto un duro más me da igual lo que esté pasando lo que esté cayendo

eso es un planteamiento que lleva al desastre

si se inicia un proyecto o no pero que algo viable en marcha

eso no lo entiende nadie y por eso yo pediría

en sentido constructivo apuntando una luz dando la solución para que el proyecto

toda esa reconversión de la vega vieja de sestao pueda llevarse adelante

que una sociedad de este tipo no busca

no debe buscar un enriquecimiento de las administraciones el objetivo es no perder dinero pero el beneficio es la revitalización

y la creación de puestos de trabajo mediante la creación de

se le ha olvidado a usted el previo

el treinta de diciembre de dos mil diez estamos en el dos mil trece y no hay hecho nada

de que desde el año dos mil siete cuando se inicia este proyecto con fecha de finalización

y en algún sitio más somos responsables nosotros yo le voy a explicar en qué ha consistido hasta ahora el proyecto ibar zaharra ha consistido en una oficina en la gran vía de bilbao a tres mil euros al mes durante estos años

más que lo que cuesta la redacción del proyecto de licitación que son ciento ochenta mil

que hemos estado pagando en este proyecto que tenía que estar terminado y con esas empresas que usted dice que estaban tan interesadas ubicadas desde el año dos mil diez

ni en el ayuntamiento de sestao haya sido responsable

nos dice que el proyecto es viable no se preocupe lo vamos a hacer viable era tan inviable que hasta ustedes saben

fenómeno que lo planteó en su día iba a vender los pabellones llave en mano es decir

no solo iban a urbanizar iban hasta a construir los pabellones y los iban a vender llave en mano lo cual

muchísimo más todo el proyecto con además la pequeña dificultad de que a lo mejor las empresas que querían ir pues esos pabellones no les interesaban me dice usted que

tiene capacidad de bloqueo y esto ya es una broma esto a mí me recuerda le voy a recordar a usted abra industrial le suena abra industrial es que en el año noventa y seis nos pasó lo mismo en el año mil novecientos noventa y seis cuando llegamos al gobierno había una sociedad que se llamaba

también con una oficina muy importante con unos sueldos de más de veinte millónes de la época que no había hecho nada de nada de nada eso sí el cien por ciento era del estado pero no mandaba en la sociedad tenía un tercio y usted me dice

tiene capacidad de bloqueo oiga por qué modificaron ustedes

en un consejo de administración en el que una de las partes pone el cincuenta por ciento por qué pusieron eso

o para que vetaran otros por qué lo pusieron si es que estamos siempre igual cada vez que ustedes gobiernan plantean algo

pero no manda y además no se hace nada y cuando digo nada es nada bueno sí perdón

que por lo visto era super necesario tener una oficina allí durante todos estos años y tres sueldos

y esto le digo que es que me suena de hace unos cuantos años con abra industrial que al final sí que lo pusimos en marcha

y le repito y en este caso va a ocurrir lo mismo va a ocurrir lo mismo pero no porque ustedes planteen que hay que hacer algo ustedes plantearon que había que hacer algo y que había que terminarlo en el año dos mil diez y estamos en el dos mil trece

aquí nadie ha planteado ni proyectos de licitación ni el previo a todo claro que es la descontaminación de los terrenos que siguen contaminados

es que no se ha hecho ni eso que tampoco hacía falta esperar mucho para hacerlo a que

aprobara todas las modificaciones urbanísticas que necesitaba pero no se preocupe se va a hacer

que basta tener un veinte por ciento o menos para bloquearlo y hay otras dos instituciones que no creo que lo hagan porque supongo que todo el mundo está de acuerdo con eso

y supongo que usted estará de acuerdo que quien pone los terrenos tendrá que cobrar

o hay dinero porque al que pone los terrenos no se le paga porque esto

y qué pasa con el cauce del río ballonti que había que incorporarlo al proyecto y que no lo hicieron no lo hicieron ustedes quiero decir

señor reyes no pretenda aquí a decir que a ustedes el paro en sestao les ha preocupado mucho durante todos estos años

en esta sociedad y al propietario del local en la gran vía de bilbao que evidentemente se les ha solucionado cualquier problema económico

se les ha solucionado absolutamente nada absolutamente nada pero también le digo no se preocupe que antes de que acabe de gobernar el partido popular estará en marcha

que nos pasó exactamente lo mismo eso sí con un proyecto viable porque usted nos ha dicho

pero tampoco es para que se arruinen verdad y el proyecto inicial que ustedes habían planteado por eso no hicieron nada es porque era irrealizable

y por lo tanto señor reyes si ustedes de verdad están interesados lo que pueden hacer

donde puedan y donde estén para que los demás que somos los que al final hacemos realidad los proyectos podamos hacer también este realidad y ya le digo no se preocupe tanto porque sí vamos a hacer y vamos a encargarnos

que es lo previo y aquí el gobierno vasco tendría que estar planteándose por qué tenemos que los terrenos contaminados exportarlos fuera porque en esta comunidad somos incapaces de tratarlos

y eso cuesta mucho dinero trasladarlo fuera y por lo tanto señor reyes en esta primera intervención

es que aunque la sepi tiene cincuenta por ciento ustedes se encargaron de que

para poder hacer nada no es que el cincuenta por ciento pueda bloquear como usted dice es que el cincuenta por ciento es incapaz de mandar o de gobernar

y aquí se tienen que poner todos de acuerdo en todo

incluido en los pagos por los terrenos aportados a la sociedad

eraikuntza bultzatzeko bi akordio interinstituzionalak sinatu ziren sestaon el objetivo que buscaba aquel gobierno municipal era clara poner

y que no valían absolutamente para nada para impulsar la llegada de nuevas empresas

para los vecinos y vecinas del municipio de sestao el primero de los acuerdos fue rubricado con la diputación foral de bizkaia para habilitar el parque empresarial

en el año dos mil siete el gobierno central el gobierno vasco

y el ayuntamiento sellaban el segundo de los acuerdos y que daba validez a la creación de la sociedad pública ibar zaharra para construir un polígono industrial en los terrenos de la antigua empresa babcock wilcox alcanzar aquellos acuerdos requirió y muchas horas de trabajo reuniones contactos y borradores hasta que por fin las dos operaciones se cerraron aquellos proyectos echaron andar más o menos a la par

del año dos mil trece y fíjense qué diferencia más abismal hay entre uno y otro de los dos proyectos seis años después el parque empresarial sestao bai

y ya se ha abierto el plazo de comercialización de las parcelas mientras que ibar zaharra aún no ha conseguido pasar de los planos lo cierto es que desde el inicio la marcha del proyecto ibar zaharra ha sido bastante más lenta de lo esperado

y dos mil once apenas se llevaron a cabo los primeros pasos de la tramitación urbanística así como los derribos necesarios para despejar el camino al nuevo parque empresarial cuatro años para derribar las antiguas naves de babcock algunos intentaron

mucho que celebrar ya que por aquel entonces el retraso era más que patente en marzo del año dos mil doce y una vez habiéndose celebrado las elecciones generales que ganó el partido popular y habiéndose formado el nuevo gobierno hubo un cambio de consejeros en el consejo de administración de ibar zaharra salieron los representantes

los delegados del gobierno de rajoy a través de la sociedad pública sepides

los problemas los representantes de sepides comenzaron a mostrar dudas con la viabilidad del proyecto a pesar de que las tres instituciones vascas que formaban parte del consejo de administración diputación foral de bizkaia ayuntamiento

y gobierno vasco querían avanzar con el proyecto sepides pues se convirtió en un frontón no aceptaron

haberse hecho ni sacar a concurso el proyecto de urbanización cuyos pliegos también estaban elaborados

se celebraron sendos consejos de administración también de la sociedad y viendo el empeño que seguían mostrando las administraciones vascas sepides cambió de estrategia y comenzó a escudarse en los pagos que se la adeudaba para continuar paralizando el proyecto esta postura enrocada ha supuesto para el municipio de sestao un mazazo tremendo

un año de trabajo dando vueltas y vueltas a un mismo proyecto que venía encarrilado despacio pero que poco a poco iba avanzando

del desmantelamiento de una buena parte del tejido industrial

tiene la obligación moral no solo de subirse al carro de ibar zaharra sino de liderar y abanderar este proyecto

lamentablemente un año perdido para sestao aunque no todos han estado de brazos cruzados durante este tiempo

de empresas para desbloquear el proyecto y poner razones encima de la mesa para poder avanzar

a pesar de este retraso aun así estamos a tiempo de engrasar la maquinaria

el polígono ibar zaharra nació fruto del consenso de cuatro administraciones públicas y nuestro grupo espera que hoy

salga apoyada por todas las fuerzas políticas hoy en este parlamento sestao necesita el respaldo de todos los grupos presentes en esta cámara nadie sobra para este proyecto hay que sumar esfuerzos

a pesar de las dudas que puede tener a día de hoy sepides tiene futuro se ha proyectado sobre unos terrenos que se encuentran situados en un lugar estratégico dentro del área metropolitana de bilbao al lado de la autopista

y con conexión por tren para mover las mercancías ocupa un espacio de centralidad dentro de la metrópoli y estamos convencidos de que las empresas mostrarán interés en trasladarse allí en el periodo dos mil ocho dos mil once

perdiendo trescientos cincuenta y siete establecimientos empresariales es decir el diecinueve por ciento de su tejido empresarial entre los municipios de la comunidad autónoma

solo pasaia ha sufrido una mayor pérdida porcentual de su tejido empresarial sestao necesita este proyecto como el comer sus vecinos y vecinas necesitan que ibar zaharra sea una realidad cuanto antes y que allí se instalen empresas que les puedan ofrecer trabajo por lo tanto más allá de la aprobación de esta proposición no de ley

yo querría realizar un llamamiento en este caso al partido popular partido que gobierna en madrid para que apueste con todas sus fuerzas por el polígono ibar zaharra para que sea sensible ante el problema de desempleo

y desbloquee el proyecto para que se puedan dar los próximos pasos eskerrik asko eskerrik asko

porque de la intención expresa de la iniciativa socialista y compartida por todos los grupos de la cámara me da la impresión y espero que por el suyo al final también de que deje de paralizarse

y se permita que se haga la licitación de los dos proyectos que llevan más de un año parados porque ustedes no lo permiten espero

y habrá sido bien empleado este tiempo lo demás

en discusiones laterales o prehistóricas pero lo que importa hoy aquí es van ustedes a apoyar

conteste por favor es decir en el sentido de ir al consejo de administración y permitir impulsar que avance la licitación de esos proyectos que llevan más de un año parado la limpieza del suelo es que está el proyecto de licitación listo hace más de un año y no se puede hacer

el consejo de administración es cierto dice que cuánto se debe por los terrenos

sea a finales del dos mil quince y en cualquier caso de manera progresiva según se incorporen empresas que vayan aportando capital por lo tanto no es eso de decir hay ocho millónes en caja a mí seis coma ocho me los den porque para empezar no son solo suyos esos ocho millónes y

es decir vamos a apoyar para que siga no voy a sacar el dinero de la caja para hacer que muera definitivamente el proyecto que esto es lo que está planteando hoy ese es el asunto bien al principio

se inició el proyecto y hay mucha diferencia entre este y el de sestao bai este tiene ahora mismo ciento sesenta mil metros cuadrados aproximadamente de suelo

y en cualquier caso las tramitaciones de estos asuntos es verdad que son todas las administraciones ciertamente de muchas administraciones y de muchos tipos estamos donde estamos que es donde estábamos hace más de un año van ustedes a impulsar

y para terminar nada más desearle mucha suerte al señor basagoiti desde un punto de vista personal porque como parlamentario se agradece mucho porque la política a veces se nos olvida

encontrarse con alguien con muchas responsabilidades como compañero de parlamento que es afable y asequible por lo tanto

le voy a volver a recordar que tenía que estar terminado en el dos mil diez

y ese sí está terminado y con empresas y el que gestionaban ustedes que es este

que cuando empezó exactamente igual sí se ha avanzado algo ahora a la representante del partido nacionalista vasco señora corrales solo le voy a matizar dice usted que la sepi es responsable del desmantelamiento industrial de la margen izquierda

la sepi es responsable de la recolocación y de casi

sin ser competente porque la competencia que la tenemos en esta comunidad autónoma es del gobierno vasco

sin ser competente y poniendo mucho dinero

mil novecientos ochenta y las reconversiones duras sí con mucho dinero desde la reconversión de los antiguos ministerios de industria desde los años ochenta y las reconversiones duras

con mucho dinero de todos los españoles muchos cientos de miles de millónes de las antiguas pesetas

que no eran viables que eran públicas que habían terminado siendo públicas porque no habían sido viables cuando eran privadas

es decir los que pusieron ahí el dinero para resolver lo que se ha resuelto han sido los que han sido y no ha sido el gobierno vasco precisamente por lo tanto vamos a ver si a la hora de plantear algunas cosas las planteamos bien porque en el tema de abra industrial por ejemplo

del dinero lo puso el gobierno de españa y en este caso que nos ocupa tal y como le acabamos de escuchar al señor reyes está planteando lo mismo porque nos dice

como siempre pero no pinta nada como siempre cada vez que ustedes hacen una sociedad de este tipo que es lo que no puede ser

si nosotros no nos liamos en absoluto lo que pasa es que nosotros sabemos

es que se pague los terrenos que era lo acordado que tenía que estar pagados en el año dos mil diez

que se haga la descontaminación de los terrenos que salga a licitación el proyecto de redacción

en la gran vía que haya tres sueldos de las características que los tienen eso es lo que vamos a apoyar

lo que le voy a asegurar es lo mismo que ocurrió en la anterior legislatura que gobernó el partido popular que algo inviable paralizado durante diez años cuando nosotros salimos había empresas colocadas

pero lo mismo que en aquella ocasión nadie nos dijo nada

pero nosotros dejamos las cosas hechas y en este caso que llevamos un año gobernando y tenemos la culpa de que el gobierno socialista en el año dos mil diez no terminara

su proyecto la culpa es nuestra no se preocupe usted nosotros sí apostamos por estas cosas pero apostamos por hacerlas bien sí claro apostamos porque no hace falta gastarnos más de

que eso ya nos lo hemos gastado por no hablar de los sueldos públicos nada más muchas gracias eskerrik asko damborenea jauna

por su discurso señor damborenea no creo que tenga entonces inconveniente de claramente la iniciativa del partido socialista como lo vamos a hacer nosotros todo lo que usted ha citado que es lo que el partido popular va a hacer es algo que actualmente se está

y en este caso sepides se está planteando con sepides un acuerdo para desbloquear y vincular los pagos adelantados es decir unas entregas a cuenta

con unos hitos en la gestión es decir habrá un pago siempre y cuando

de descontaminación obras que podían haberse licitado señor damborenea en marzo del año dos mil doce porque estaban los correspondientes pliegos

así como esperemos también que en un plazo brevísimo de tiempo se licite la redacción del proyecto de urbanización cuyos pliegos también llevan elaborados desde marzo del dos mil doce por lo tanto

eso no es cierto había trabajo avanzado

unos nuevos consejeros en una nueva sociedad hizo que durante un año sí que no se haya avanzado nada espero que para el próximo consejo de

sea antes de finalizar este mes de mayo

acordado una serie de cuestiones todas las que usted

avance vuelvo a hacer el llamamiento en este caso al partido popular para que en el consejo

siga paralizando que sea sensible con el problema de desempleo que tiene sestao tanto al partido popular partido que gobiernan en madrid como

que tiene representación en el ayuntamiento de sestao gobierno vasco diputación así como

esta sociedad este polígono industrial es muy importante

y que de una vez por todas entre todos consigamos desbloquear este proyecto y que podamos ver que se dan pasos en un plazo de tiempo eskerrik asko

egun on señor lehendakari buenos días señor basagoiti buenos días señorías si echamos la vista atrás si nos detenemos a analizar las últimas tres décadas en el país vasco

entre otras muchas cosas si algo ha condicionado en cierta manera nuestra forma de ser nuestra forma de actuar si algo ha condicionado al conjunto de la sociedad

el miedo ese temor que ha conseguido dominar emociones anular probabilidades

opciones y ese miedo ha sido el temor el sentimiento que ha neutralizado y configurado muchas de las conductas de la sociedad vasca

libremente más allá de la cuadrilla o incluso en ella

el miedo a participar el política y no digamos ya a hacerlo en el partido popular

o en alguna otra formación el miedo en euskadi

el miedo que provocaban también quienes desde su entorno eran chivatos fieles a la causa ese miedo que lo tapa todo

donde solo impera un discurso donde solo se permite un discurso donde se silenciaban las voces discrepantes donde

la verdad el miedo en definitiva que es el que atenaza el discurrir natural de las cosas dejando

para aquel que ejerce el miedo el miedo ideado y jaleado

que nos ha ido sacudiendo a los vascos y que nos hemos ido también sacudiendo los vascos lentamente con mucho esfuerzo plantando cara para no dejarnos dominar porque aunque les cueste entender a algunos la opinión pública la forman quienes hablan pero también la forman quienes callan

va desapareciendo y va desapareciendo porque hemos ganado a eta pero aún no hemos desterrado del todo el miedo y una de sus derivadas que es la mentira que es el odio

precisamente en este momento que empecemos a mirar al futuro situando la realidad en sus justos

hoy que nos estamos sacudiendo el miedo que empecemos a situar la realidad en sus justos términos por eso es necesario precisamente ahora momento en el que podemos empezar a ver un futuro mejor para euskadi en el que recuperamos

por eso es especialmente importante ahora que rechacemos aquello que nos aleja de la verdad porque no nos hace ser una mejor sociedad

como se dijo en esta cámara hace bien poco que algunos utilicen sistemáticamente subterfugios del lenguaje para llamar presos políticos

aquí en esta tierra y en este parlamento

político y lo que son son asesinos de manual

conceptos que una y otra vez se repiten en la política vasca

que no solo confunden a la opinión pública y a los vascos sino que hacen daño a los vascos hacen daño a nuestra sociedad hacen daño al sistema democrático

todos los partidos políticos vascos la obligación de ir despejando un horizonte

y de verdad en euskadi la obligación de construir un mínimo común denominador

sólido inequívoco a partir del cual poder ir superando tantos años de violencia terrorista de eta un mínimo común denominador

que nos ayude a reconstruir nuestra dañada sociedad y que quienes nos sucedan sepan que a pesar de los miedos y de las cobardías que a pesar de los errores que a pesar de los silencios de las miradas para otro lado

por la obligación pedagógica de llamar a las cosas por su nombre los presos de eta no son presos políticos y no lo son porque no están condenados por sus ideas no están condenados por defender una idea

están condenados por asesinar por extorsionar por matar las víctimas de eta sí son víctimas políticas las víctimas de eta sí son víctimas políticas

porque fueron asesinadas en nombre de un proyecto político totalitario es más

todos somos víctimas políticas de eta porque nos quisieron matar

o intimidar en nombre de un proyecto político totalitario y el respeto al pluralismo y a la diversidad social es la prueba de fuego

matar en nombre de un proyecto político pone de manifiesto su totalitarismo y no queremos que eso vuelva a reproducirse en euskadi por eso la aprobación de esta proposición no de ley es un paso obvio quizás demasiado obvio pero necesario para construir un futuro mejor

bastantes cosas muy confusas en la política vasca para que se llame a cada cosa

y dejar claro que en españa dejar claro que en euskadi que en nuestro estado de derecho no existen presos políticos

en el país vasco no se limita en exclusiva al terrorismo

de la violencia sino también a la existencia de una subcultura incompatible con los valores democráticos una cultura política que se sirve instrumentalmente de las instituciones democráticas que ocupa

no podemos sustentar nuestro futuro sobre la fragilidad

como no podemos estar esperando y empujando a quienes ni creen ni están dispuestos a defender la pluralidad y ampararla

con entusiasmo la cordura rectificar errores de volver al consenso y a la moderación atrás quedaron espero aquellos tiempos en los que el miedo y la deslealtad institucional

por eso si algún voto me parece hoy especialmente importante es el suyo señor lehendakari

primero porque es mi lehendakari porque es nuestro lehendakari y yo espero de mi lehendakari

que defienda el estado de derecho que a usted le legitima para estar donde está y segundo porque es bueno para el país

más lejos de bildu y más cerca de los demás que es bueno que quien no reconoce el estado de derecho se sienta solo

y que quienes reconocemos el estado de derecho y nos sentimos amparados por él y nos legitima juntos juntos en la denuncia de la injusticia del totalitarismo pero también en defensa de la verdad y por eso espero

seamos capaces y sean capaces de consensuar algo tan simple tan obvio y tan de cajón como que en este país en españa

a nadie se le encarcela por pensar de una determinada manera aquí se encarcela

que es lo mismo que decir que se encarcela por asesinar y eso

si gracias presidenta buenos días a todos a nosotros nos parece una absoluta vergüenza y algo

determinadas cosas que han ocurrido en euskadi determinadas cosas que siguen ocurriendo en euskadi y determinadas cosas que se dicen y se hacen

el mismo día de hoy a nosotros nos parece una absoluta vergüenza y algo absolutamente inaceptable que se llame presos políticos a los presos de eta me parece algo absolutamente inaceptable y una vergüenza que eh bildu

a los presos de eta y me parece incluso inaceptable que se permita que en esta cámara eh bildu siga llamando presos políticos a los presos de eta y me parece una vergüenza y me parece algo absolutamente inaceptable que se intente impedir la detención de delincuentes como ocurrió ayer

una vergüenza y me parece algo absolutamente inaceptable que se porten en sede parlamentaria camisetas como ahora mismo estamos viendo por los representantes de eh bildu camisetas que apoyan que se impida la detención de delincuentes a nosotros nos parece algo absolutamente inaceptable y una vergüenza

a la sociedad democrática y en concreto y especialmente a las víctimas del terrorismo no podemos olvidar y no vamos a olvidar como algunos pretenden

que eta es una banda terrorista que provocó más de ochocientos cincuenta asesinados que provocó decenas de secuestrados y miles de heridos perseguidos y extorsionados cuando eh bildu y la izquierda

se refiere a los presos de eta como presos políticos está diciendo que los presos de eta encarcelados no deberían seguir presos

que son inocentes es decir que están injustamente encarcelados es decir que no cometieron delitos es decir que sus crímenes estuvieron bien todo esto es lo que está diciendo eh bildu y servicios auxiliares

en su conjunto cuando define a los presos de eta como presos políticos es decir cuando eh bildu incluso en este mismo parlamento se refiere a los presos de eta como presos políticos está justificando

españa como todo el mundo sabe es una democracia y no hay presos políticos en españa y quien diga que los presos de eta son presos políticos está justificando

unas ideas y los presos de eta no están en las cárceles por defender unas ideas sino por extorsionar por amenazar por asesinar

en el código penal insisto por tanto en algo que es una obviedad para los demócratas españa es una democracia y en ella no hay presos políticos y quien diga que los presos de eta son presos políticos está pretendiendo justificar a eta por tanto

y estamos de acuerdo obviamente con la enmienda planteada y transada por el grupo popular y el grupo socialista en todo caso en nuestra opinión se queda corta

nuestra enmienda nosotros efectivamente vamos más allá con nuestra enmienda añadimos que la pretensión de justificar a eta al utilizar el término presos políticos

debe ser atajada por los tribunales de justicia y que merece además del desprecio político la aplicación estricta de la ley de partidos ley que plantea la ilegalización de aquellos partidos políticos que no condenen a eta o justifiquen sus crímenes ley que a día de hoy

está en suspenso además en esa enmienda proponemos instar al gobierno de españa a incluir en el código penal el delito de negacionismo de los crímenes terroristas de modo que se ataje y se ponga freno a la utilización por determinadas formaciones del término o expresión presos políticos para referirse a los miembros de la banda terrorista eta para pretender justificarla como si sus crímenes

o fueran justificables es decir lo que queremos y lo que defendemos también con nuestra enmienda y lo que defendemos en este parlamento es que sea delito negar

que españa es una democracia y es una obviedad que en españa no hay presos políticos y es una obviedad que en españa se pueden defender todas aquellas ideas que sean democráticas sin otro límite que el respeto a la legalidad vigente y es una obviedad que cuando eh bildu

justificar retrospectivamente los crímenes cometidos por eta y esto es algo que a nosotros nos parece y que los tribunales de justicia no deberían permitir por todo esto a pesar de que efectivamente y finalmente como es razonable votaremos a favor de la enmienda transaccional que han firmado el partido popular y el partido socialista de euskadi por todo esto nosotros mantenemos nuestra enmienda de totalidad que pensamos que va más allá

y creo que también debería ser votada por los partidos políticos democráticos presentes en esta cámara nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna

inolako justifikazio edo zurikeriarik gabe konstatazio hutsa amnistía internacional parece anteponerse a este debate cito los gobiernos suelen afirmar que en su país no hay presos políticos sino únicamente presos encarcelados en aplicación de las leyes penales ordinarias sin embargo

califica de políticos casos como los descritos y emplea las expresiones juicio político

para referirse a ellos y es que solo faltaría que el estado español no guardara una mínima apariencia jurídica en los procesos

a estas personas por supuesto que lo ha hecho procurando encajar hechos en una tipificación jurídica

de una apariencia de una retórica legal qué menos pero ni tan siquiera así se cumple esa apariencia un jurista alemán que participó de observador en el conocido juicio dieciocho barra noventa y ocho en la audiencia nacional decía hemos conocido juicios sin pruebas es la primera vez que vemos un juicio

no había hechos que agrediesen bienes jurídicos protegidos por el código penal pero era necesario establecer una pena

del asunto que hoy nos ha traído el pp precisamente el pp no es una mera cuestión interpretativa no atañe a la libertad de opinión o cómo se expresa esta opinión

se pueda debatir sobre este término lejos de otras actitudes vergonzosas que hemos podido presenciar en este parlamento hoy espero que la palabra se imponga ante la pataleta en el escaño el debate de ideas prevalezca sobre los gritos

hoy no tengamos que presenciar con vergüenza enfrentamientos impostados con la presidencia de esta sala por obligar a otros que se expresen

le place hoy esperemos que no haya ya las habituales solicitudes de sanción querellas contra parlamentarios porque hoy hablaremos de lo que ustedes habitualmente niegan que se hable hoy hablaremos de la asistencia de presos políticos hecho que con naturalidad encontrará

enfrentadas contrarias pero también favorables decía que lamentablemente no es mera cuestión interpretativa porque tenemos motivos para pensar que en esta iniciativa

hay tribunales que desde la lejanía apostados como francotiradores esperan una resolución como la que hoy nos trae el pp tanto la audiencia nacional como el tribunal supremo están deseosos de una oposición de este parlamento de rosca nueva a la represión judicializada que en los últimos tiempos está enfocada contra la solidaridad con los presos vascos esa campaña que arrancó con las fotos de presos y que hoy busca incluso llegar

una palabra político alguien lo ha traído ha hablado ya de ilegalizaciones ha hablado de crear nuevos tipos penales en este nuevo tiempo son políticos porque son políticos en su motivación de la misma manera que solo se puede considerar político el contexto las circunstancias

que estaban y están a la raíz de los hechos la polémica se ha dado en sede política las declaraciones sobre los hechos que se han llevado a cabo han sido realizados por responsables políticos siendo estas así mismo declaraciones políticas es político el tratamiento comunicativo simbólico

son políticas así mismo sus consecuencias

semper las víctimas son políticas y eso precisamente le costó

de querella contra ella misma más aún hecho determinante es político el trato que reciben en su detención en su enjuiciamiento es político su castigo es política las medidas que se les aplican una vez en prisión políticas profundamente desiguales con respecto al resto de presos

habitual reconocida tratar igual al que es igual y tratar desigual al que es desigual no se puede entender tratar desigual a una categoría de presos y al mismo tiempo pretender que son iguales al resto

que su tratamiento sea igual al resto de los presos al común de ellos sin embargo se justifica el trato desigual parcial

derechos y establece profundas injusticias al tiempo que se le niega razón y motivación a ese trato será político así mismo la resolución de todas estas consecuencias y de todas estas circunstancias algo en lo que se ponen todavía palos en las ruedas

misma cámara posiciones que hoy nos traen nos muestran la involución que se está dando permanentemente esa pendiente

señora presidenta señor lehendakari consejeros consejeras señorías por mucho que

y eh bildu se empeñen en insistir en que

esto no es cierto ni en euskadi ni en el conjunto de españa desde que se instauro la democracia hay presos políticos y no existen presos políticos

en una democracia consolidada en un régimen de garantías

en euskadi y el resto de españa no existen presos políticos y así lo reconocen no solo los tribunales de justicia también el parlamento europeo

o el consejo de europa españa es una democracia homologable en libertades y derechos al conjunto de las democracias

dictó sentencia referida a la ley de partidos y a la legalización

amparo y cobertura a la violencia que nuestra legislación no solo era

sino lo que era más importante que era imprescindible para defender la democracia y el estado de derecho el consejo de europa aprobó una resolución hace

los encarcelados por crímenes terroristas no serán considerados presos políticos si han sido perseguidos y condenados por sus crímenes de acuerdo con las legislaciones nacionales que como en el caso de españa cumplen con todas las garantías judiciales y procesales propias de un estado de derecho por tanto reitero por mucho que ustedes se empeñen en hablar de presos políticos ni en euskadi

lo que ha habido es personas que por decisión o colectiva tomaron la decisión de cometer actos terroristas asesinatos muy graves con la excusa de reivindicar una cuestión política en vez de defender esta por vías democráticas o negándose a defender esta

lo que ha habido en euskadi son personas condenadas y encarceladas por ejecutar ordenar asesinatos

es personas que jaleaban daban cobertura amparaban o justificaban las actividades de eta sus actividades terroristas esta es la verdad de lo ocurrido en euskadi que hay personas en prisión condenadas por pertenecer a eta y cometer asesinatos y delitos muy graves

no puede ser de otra manera tienen que ser perseguidos por las diversas policías para que sus autores sean detenidos y condenados

de justicia que hayamos conseguido que eta abandone todas las actividades terroristas no implica en ningún caso que los miembros de eta u otras personas que dieron cobertura y apoyo a eta que tengan cosas pendientes por la justicia queden impunes no va a ser así

como dijeron ayer que el tiempo de las detenciones ha pasado qué quieren decir con eso que quienes

con la justicia que quienes tienen que ser llevados a cumplir

que tiene que haber borrón y cuenta nueva con la pretensión de hablar de presos políticos se producen

ético y democrático como la que ocurrió ayer que la portavoz de eh bildu otros parlamentarios y dirigentes de esa coalición

intentaran nada menos que evitar que fuera detenida una persona que fue condenada por cinco años a prisión por colaborar con eta una persona condenada a cinco años de prisión

y ustedes intentaron que no fuera detenida qué quieren ser ustedes quienes administren justicia decidir quién puede ser detenido o no

esa es la forma que ustedes tienen de entender la democracia pero esta actitud sumada a otros comportamientos recientes por ejemplo la presencia de dirigentes de eh bildu en el homenaje a un dirigente de eta a un terrorista

ponen de manifiesto hasta qué punto a ustedes le queda

para alejarse definitivamente de eta y asumir plenamente en la práctica las reglas de juego de la democracia miren los presos

por decisiones de otros ellos tomaron una decisión de forma individual o colectiva para alzarse en armas contra la democracia y el estado de derecho

y esta también es una realidad y una verdad que ustedes tienen que tener en cuenta la verdad

comprendemos que le resulte incómoda pero ustedes no van a poder rescribir la historia ustedes quieren hablar de presos políticos o de conflicto político en un intento claro de pretender exculpar la responsabilidad

cometieron actos terroristas o les dieron amparo y cobertura

en nombre de una presunta causa política es verdad que con el fin de imponer su proyecto totalitario y sus pretensiones al conjunto de la sociedad vasca pero ello lejos de descargarles de responsabilidad a los miembros de eta o a quienes le dieron apoyo y cobertura

señorías en euskadi se puede ser de derechas de izquierdas conservador

centralista autonomista o independentista en euskadi se pueden defender todas las ideas siempre que se haga ajustado esa defensa al respeto a las reglas de juego y por medios legales precisamente porque se pueden defender todas las ideas incluidas también las ideas independentistas es por la que el mundo de batasuna

a la actividad política de forma legal y tienen representación en esta cámara y en otras instituciones

asumió incluso aceptando la ley de partidos y que ahora niegan a otros el propio secretario general

se acoge a todos los instrumentos de la legalidad para salir de la cárcel lo antes posible tiene todo su derecho porque vivimos una democracia pero me reconocerán que

esa misma actitud se le niega a los presos de eta que por cierto ustedes dicen que defienden para que puedan aquellos que lo deseen acogerse a los beneficios penitenciarios a la legalidad penitenciaria para tener beneficios penitenciarios y recorrer el camino de reinserción

que es una forma curiosa de defender a los presos mientras ustedes pisan moqueta los presos de eta los que dicen defender se pudren en las cárceles y ni siquiera pueden acogerse a los beneficios penitenciarios porque entre otras cosas

termino ya señorías termino insistiendo en que

que en una sociedad democrática en una sociedad decente no se puede permitir que se trate de diluir los crímenes o

de delitos que alguien haya cometido o las responsabilidades de pasado de haber amparado o justificado la violencia terrorista no podemos trastocar la verdad

a las generaciones venideras un legado de amnesia tenemos que trabajar porque se asiente la verdad la memoria la reparación y la justicia y es verdad que todos deberíamos ser capaces de mirar al futuro pero mirar al futuro y trabajar juntos para consolidar una sociedad en paz y libertad

solamente se puede hacer si se hace sobre sólidos sobre sólidos suelos éticos y democráticos y todos deberíamos para trabajar

seguir reclamando a eta que se disuelva definitivamente y todos deberíamos tener claro algo muy importante que

los conflictos en democracia nunca se resuelven por medios violentos la transacción que hemos acordado con el grupo popular recoge claramente

políticos lo recoge con toda contundencia yo espero que todos estemos a la altura de las circunstancias y especialmente

y el lehendakari que emite su voto en este parlamento también ratifique con su decisión

consensos básicos porqueafectan a aspectos sensibles para la convivencia social y política deben remitirse por responsabilidad a la ponencia de paz y convivencia ustedes representantes del partido popular y de upyd tienen las puertas abiertas a la citada ponencia

dialogar no significa estar de acuerdo con todo y con todos nuestro pueblo tiene que tejer consensos básicos y como representantes de este pueblo es nuestra obligación intentarlo una y otra vez

los presos de eta han sido juzgados y condenados por la comisión de delitos relacionados con la actividad violenta terrorista de eta eta siempre ha querido condicionar y alterar la situación política

al inicio del debate de ahí que sean personas que con objetivo político delinquen

su pertenencia a eta hace que su trato sea diferente su motivación en la comisión de delitos por los que han sido juzgados y condenados los hace diferentes

el señor arzuaga ha dicho una frase que

demoledora hoy espero que la palabra se imponga dónde ha estado usted

dónde han estado ustedes estos años cuando los demás intentábamos

por qué ahora sí quieren que la palabra se imponga y antes justificaban

para venir a darnos lecciones de democracia en esta cámara

tenemos que asistir impasibles a lecciones de democracia de quienes han estado escondidos en el mejor de los casos o justificando en el peor de los casos que aquí no se pudiere imponer la palabra en euskadi

impasibles a ese insulto a la inteligencia y a la democracia en esta sociedad ustedes tienen un problema

todos tenemos problemas en la vida ustedes tienen uno muy serio que es con los presos

se lo creyeron y asesinaron se les detuvo

y ahora quienes jaleaban quienes ahormaban políticamente el terrorismo

gobiernan instituciones importantes como la diputación foral de gipuzkoa el ayuntamiento de san sebastián y otros muchos

con sus ordenadores portátiles con sus camisetas porque los que están en la cárcel

los presos son su problema no es el problema de la sociedad vasca son

y con expresiones como presos políticos lo que quieren es limpiar sus conciencias por un lado y protegerse de la indignación de los presos por otro

no es el problema de los demás no podemos aceptar la mentira para salvarles a ustedes la cara no podemos aceptar la mentira señora vaquero porque claro que influye en el futuro claro que es fundamental para construir un futuro mejor hacerlo desde la verdad

claro que no podemos tolerar que en euskadi alguien quiera dar una patina de justificación al terrorismo

de político porque ustedes además insultan a los presos políticos que hay a lo largo y ancho del mundo que viven en países en los que no hay libertad que están encarcelados esos sí por pensar y por defender ideas políticas esos sí

por asesinar por cometer delitos por extorsionar no por defender una posición política

dice literalmente durante años amnistía internacional ha condenado los graves abusos contra los derechos humanos cometidos por eta condenado

cualquier argumento u objetivo que pretenda justificarlos

que no puede haber impunidad para estos graves abusos de derechos humanos cometido por eta y usted en un ejercicio de trilerismo político lo que vienes a contarnos que amnistía internacional dice no sé que cosa sobre los

lo dice de aquellos que han sido encarcelados por defender sus posiciones políticas en regímenes totalitarios por cierto régimen que nos quiere imponer

y que hemos sido capaces de sustentar quienes nos hemos enfrentado a eta porque si por ustedes fuera aquí no habría democracia porque hubieran ganado las pistolas la bomba y el totalitarismo no nos puede venir a dar lecciones

cruce el puente de la vergüenza a la democracia cruce el puente de la mentira a la verdad

porque el estado de derecho irá a buscarles al puente si ustedes no lo cruzan no les quepa la menor duda aquí se cumple la ley

y ustedes por el mero hecho de haberse convertido en no sé qué cosas ni nos pueden dar lecciones ni tienen privilegios en esa ley y en ese estado de derecho que lo tengan bien claro y eso no va a cambiar nos duele profundamente que el partido nacionalista vasco

por omisión acepte que en euskadi que en españa existen presos políticos me duele profundamente señor lehendakari

de verdad necesitamos una mesa una ponencia

de justificar que necesitamos una ponencia política en la que dejemos claro que aquí no existen presos políticos para eso esa ponencia política para de si existen en este país presos políticos o no en eso dedicamos el tiempo los políticos es tan difícil entender y aprobar y compartir que en un estado de derecho no existen presos políticos un violador

a que no es un violador un maltratador

por una relación doméstica desviada

es un maltratador y le censuramos y no toleraríamos que alguien pretendiera rebajar su gravedad poniendo adjetivos un preso de eta no es un preso político

y está en la cárcel por asesinar lo que lamento señor lehendakari es que usted hoy

no vaya a defender esto muchas gracias eskerrik asko semper jaunak